ezagunena egin dena edo los alumnos del país vasco sabrán quién era agustina de aragón porque la historia de españa

troncal con unos contenidos establecidos por el ministro de educación zein

señor lehendakari nos proponía eh bildu celebrar en el parlamento vasco un debate monográfico en sesión plenaria para la definición de las bases y líneas de trabajo para hacer frente a la lomce comenzaré diciendo que nosotros

y lo hemos hecho en el principal lugar donde debe hacerse es decir en el congreso de los diputados y lo hemos hecho

y de manera rigurosa explicando a fondo nuestra posición sobre la materia explicando los problemas del sistema educativo español y proponiendo medidas para su mejora ahí está nuestra enmienda de totalidad que defendimos

nuestras enmiendas parciales y ahí está también nuestro voto contrario a esta ley más allá del ruido mediático más allá de la publicidad

más allá de las posiciones sectarias de unos y de otros más allá de la brocha gorda más allá de los espectáculos habidos

hemos debatido de manera seria y rigurosa de un asunto que nos parece fundamental y ya digo que los hemos hecho con responsabilidad y con argumentos

la mejora de la ley discutiendo cada enmienda parcial una vez rechazada la enmienda de totalidad que presentamos con el objetivo siempre

terminaría y terminará provocando participando en la comisión participando en todas las reuniones de la ponencia y logrando incluso

nos aceptara algunas de las enmiendas parciales en concreto una enmienda para que se reconozca al profesorado como autoridad pública

o una enmienda para que el castellano pueda ser lengua vehicular en cualquier parte del país entre otras enmiendas que fueron aceptadas nosotros hemos sido muy críticos con la lomce la lomce no es la ley que necesitamos

es coyuntural no hace mejoras imprescindibles y consagra graves vicios políticos

por la obsesión del gobierno de españa por luchar contra el déficit público

ha renunciado a reformar el modelo pedagógico vigente allí donde más daño hace la etapa primaria que se queda como estaba

renuncia ha renunciado al espacio español de educación obligatoria

maltrata las humanidades y las enseñanzas artísticas

no solo no conseguirá resolver los problemas educativos expone explica en su exposición de motivos sino que crea problemas nuevos como la introducción de la religión evaluable la supresión de educación para la ciudadanía la segregación por sexos subvencionada o el favoritismo descarado a los centros privados

no es la ley que necesitamos de ahí nuestra enmienda de totalidad las treinta y tres enmiendas parciales que presentamos y defendimos

minimizar daños y nuestro voto en contra a pesar de que algunas de nuestras enmiendas más bien pocas fueron aceptadas por el gobierno dijimos desde un principio que efectivamente era necesaria una ley educativa que atajara y resolviera los problemas educativos existentes y que intentara mejorar el sistema en su conjunto dijimos que era necesaria una ley que fuera capaz de sustraerse al habitual vaivén político partidista

la inestabilidad del marco legal del sistema educativo español con cuatro leyes educativas aprobadas en apenas veintitrés años dijimos que una buena ley de educación debería servir al menos para veinticinco treinta años

en términos tales que los cambios hechos al desarrollo legislativo de la ley no obligaran a la reforma del conjunto de la ley sino solo a sus normas derivadas

inestabilidad legislativa en la educación es consecuencia de la preeminencia de criterios político ideológicos sobre los propiamente educativos y que esta

tan característico del partido popular y del partido socialista en los últimos años ha sido algo muy negativo para el desarrollo de la educación en el conjunto de españa españa es uno de los raros países de la unión europea que ha visto empeorar sus resultados durante los últimos años el fracaso escolar

han aumentado en este periodo y duplican la media europea la inversión educativa en españa sigue estando por debajo de la de los países más avanzados

europea fue del cuatro coma nueve por ciento el gasto público fue sin embargo superior once coma nueve por ciento

uno de los problemas de la educación en españa es una distribución competencial que ha ido fragmentando el sistema educativo español subsistemas en algunos de los cuales se han implantado políticas de imposición lingüística que tratan a la lengua común como si fuera una lengua extranjera negando incluso

en la lengua materna la división del espacio educativo en diecisiete subsistemas ha favorecido la instrumentalización de la enseñanza

e identitarios claramente disgregadores en detrimento de una formación de ciudadanos basada en los principios éticos y políticos comunes

con independencia de su lengua materna lugar de residencia o creencias religiosas o ideológicas aunque la cesión de las competencias educativas a las comunidades autónomas

en la creencia de que la gestión más cercana redundaría en una enseñanza de más calidad el hecho es que las diferencias de resultados entre comunidades autónomas no han disminuido

secular los resultados obtenidos en las pruebas internacionales de evaluación exterior redundan en este diagnóstico al dibujar un sistema educativo mediocre y mediocrático en lugar de meritocrático que ha perseguido más

que promover el talento individual en efecto mientras que españa no está muy alejada de la media

ocde en algunas materias como ciencias matemáticas

en dos variables de importancia el mayor fracaso escolar y abandono temprano y el escaso porcentaje de alumnos con resultados superiores a la media además la tasa de repetición de curso es la más alta de la unión europea el treinta y uno por ciento de los alumnos de quince años habían repetido algún curso

estos resultados negativos provocados evidentemente por los partidos políticos que han gobernado españa en las últimas décadas es decir el partido popular y el partido socialista invitaban e invitan a pensar que el sistema educativo español tiene varios puntos débiles se trata de un sistema poco eficaz

escritura y matemáticas en la enseñanza primaria esenciales para el progreso de la educación en las siguientes etapas y especialmente en los mayores niveles de rendimiento este déficit de eficacia es una consecuencia muy probable de un modelo pedagógico equivocado o a veces mal empleado

conviene insistir en que es imposible enseñar lo que se ignora y que la reflexión teórica derivada del postulado aprender a aprender a veces convertido en dogma no

a enseñar se trata de un sistema poco orientado a la promoción del talento mucho más interesado en conseguir ciertos objetivos estadísticos medios del grupo escolar se trata de un sistema poco acostumbrado a la evaluación externa de los resultados como sistema de mejora del rendimiento y utilización de los recursos y refractario

positivos se trata de un sistema aparentemente muy descentralizado pero rígido burocratizado e intervencionista en el interior de los diecisiete

administrativas curriculares y lingüísticas se trata de un sistema que posterga la formación profesional como alternativa prestigiosa hasta aquí los problemas generales de la educación en españa que explican la necesidad que había de aprobar una nueva ley de educación que reformara el sistema educativo evidentemente no esta ley que criticamos de manera contundente pero sí pensamos

de reformar la educación en españa de cambiar el sistema ciertamente en euskadi estamos mejor que en otras comunidades autónomas en algunos temas abandono escolar temprano fracaso escolar y formación profesional

en todas las comunidades autónomas y por otro lado cabe señalar que euskadi

en gasto por alumno sin que esto tampoco tenga una traslación mimética en los resultados educativos por lo demás tenemos un sistema educativo lastrado

y claramente mejorable sin olvidar que la obligación

la obligación de cualquier gobierno de españa es articular un sistema educativo coherente y garantizar una formación de ciudadanos basada en los principios éticos y políticos comunes a todos los ciudadanos con independencia de su lengua materna lugar de residencia o creencias religiosas o ideológicas analizando todo esto concluimos que efectivamente hacía falta una nueva ley de educación

estos problemas es esta la ley wert evidentemente no

era necesario sigue siendo necesario una ley con el mayor consenso posible con vocación de perdurabilidad elaborada sin sectarismos políticos y pensada en el interés general visto el proyecto de ley presentado inicialmente por el gobierno upyd y reivindicó una serie de objetivos a alcanzar y una serie de medidas para alcanzar esos objetivos que nosotros planteábamos objetivo uno alcanzar

exige en nuestra opinión la rectificación del modelo pedagógico vigente adoptando un currículum más flexible que se adapte mejor a las necesidades de cada alumno

de los escolares y no al contrario con una atención especial a los escolares más atrasados por cualquier razón la disminución del número de asignaturas

expresión oral y escrita matemáticas y ciencia básica e inglés respecto al bachillerato y decíamos que es preferible mantener tres modalidades humanidades y ciencias sociales ciencias de la naturaleza y tecnología y artes y la promoción

a catorce años y eliminarse la mención al fracaso escolar para acceder a ella y el refuerzo de la disciplina en los centros

la condición de autoridad pública y mejorar la selección del profesorado de todas las etapas escolares promoviendo a la docencia a los graduados mejor cualificados potenciando la formación práctica en los centros escolares mediante un sistema similar

y mayor autonomía para los centros y potenciar la competencia entre centros con incentivos materiales y profesionales para aquellos que mejoren sus propios resultados estas medidas entre otras muchas ya digo para el modelo educativo más eficaz objetivo dos alcanzar un sistema público de calidad que priorice el desarrollo y la mejora de la red pública como columna vertebral del sistema sin prejuicio de la existencia de redes concertada y privada pero con un control administrativo

en los centros privados concertados cuyo profesorado también debe ser seleccionado por métodos de concurso similares a los de la red pública los centros que practiquen la educación segregada por sexos no deberían ser admitidos al régimen de conciertos al tratarse

en una moral particular que modifica materialmente el proyecto educativo público objetivo tres un currículum integrador

y por tanto con asignaturas orientadas al cumplimiento del precepto constitucional según el cual la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y los derechos y libertades fundamentales por tanto el currículum

asignaturas confesionales ni contenidos orientados al adoctrinamiento religioso ideológico o identitario por el contrario debería haber una materia específica sobre educación ética y valores cívicos objetivo cuatro potenciar el sistema educativo común nacional y reconocer el reconocimiento real de la libertad de elección lingüística en las comunidades bilingües

y con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades la legislación educativa básica competencia del estado y de las cortes españolas debería aspirar a la mayor coherencia y convergencia posible de los currículos educativos autonómicos las barreras territoriales de acceso y facilitando la movilidad del profesorado y del alumnado por todo el territorio nacional lo que implica la adopción

aunque la gestión y parte del desarrollo curricular siga correspondiendo a las administraciones autonómicas y con independencia de la lengua vehicular de las líneas educativas en conclusión explico a continuación en algún caso nuevamente las razones por las cuales

no se revisa el modelo pedagógico mantenido en el tiempo y por tanto no se resuelven los

el abandono temprano el bajo nivel de conocimientos se mantiene la existencia de diecisiete subsistemas autonómicos lo cual crea problemas de financiación igualdad y evaluación nos oponemos también porque es básicamente la loe con algunos cambios

con lo cual en fin seguimos necesitando una nueva ley que trate de resolver los graves problemas educativos que siguen existiendo

nació viciada por los habituales prejuicios que anteponen conveniencias

y convicciones de partido a criterios propiamente científicos y sociales mientras por otra parte renuncia a profundizar en los cambios necesarios del modelo

no mejora la selección y la situación del profesorado

no fuera el requisito imprescindible para cualquier mejora educativa además el profesorado de los centros públicos tendrá menos autonomía para decidir asuntos que debería decidir

evaluable la supresión de educación para la ciudadanía la todavía mayor intromisión de las comunidades autónomas que serán las que finalmente nombren al director del centro

o la relajación de las exigencias y el control a los centros privados concertados lo que no deja de ser un favoritismo descarado o la separación por sexos subvencionada porque contradice el principio público de coeducación una cosa

de elección y otra cosa es la libertad de discriminación

es claro que el estado no debe subvencionar centros escolares a los que no pueda acceder cualquier niño o niña aunque tampoco debe prohibirlos si su enseñanza no es inconstitucional por tanto consideramos que era necesario

aunque no en el sentido en que se ha hecho no compartimos el contenido

muy críticos con la lomce seguimos siendo muy críticos

nos parece una ley reaccionaria que pierde una nueva oportunidad de mejorar la educación en españa

renuncia al espacio español de educación obligatoria la lomce maltrata las humanidades y las enseñanzas artísticas

diecisiete subsistemas educativos con su tendencia al alejamiento curricular dificultando además la movilidad geográfica de alumnos y docentes en definitiva

y por eso nosotros hemos votado en contra de esta ley y por eso hemos sido muy críticos con esta ley ante esta situación el gobierno vasco

debería analizar seria y rigurosamente los errores del sistema y las debilidades de la educación en euskadi y a partir de ahí y respetando en todo caso

proponer mejoras para disminuir la tasa de abandono educativo temprano para fomentar la empleabilidad para mejorar el nivel de conocimientos en materias

para incrementar la autonomía de los centros docentes para mejorar el aprendizaje de las lenguas extranjeras para introducir con contundencia y con claridad

todo lo que debería hacer el gobierno vasco en lugar de hacer llamadas más o menos soterradas a la insumisión o al incumplimiento de la ley y desde luego acabar con cualquier propósito de adoctrinamiento ideológico e imposición de los postulados

nacionalista algo que históricamente se ha llevado a cabo en euskadi es realmente lo que los nacionalistas han pretendido pretenden y seguirán pretendiendo y a lo cual también nos oponemos de manera contundente

del currículum vasco o mañana a través de la modificación de la ley de educación no hace mucho decía la consejera de educación del gobierno vasco que uno de los propósitos del gobierno vasco era defenderse de

así lo decía la propia consejera de educación nosotros proponemos defendernos pero defendernos también especialmente en euskadi de los nacionalistas vascos y sus ansias de adoctrinamiento ideológico manipulación histórica

a través de la educación en euskadi por tanto nosotros reclamamos y seguimos reclamando una ley educativa

educativos existentes y que mejore el sistema en su conjunto y que obviamente mejore también los problemas existentes en euskadi que haberlos una ley educativa que sea capaz de sustraerse al habitual político partidista y que piense realmente y de una vez por todas en el interés general una ley educativa con amplio consenso y con vocación de perdurabilidad una ley educativa laica

una ley educativa basada en los principios éticos y políticos comunes

con independencia de su lengua materna lugar de residencia o creencias religiosas o ideológicas una ley educativa que configure un sistema coherente en todo el estado que impida la instrumentalización de la enseñanza al servicio de adoctrinamientos ideológicos identitarios claramente que es algo habitual que los nacionalistas vascos han hecho han pretendido hacer y han hecho y seguirán pretendiendo hacer también aquí en euskadi en fin lo que no tenemos este tipo de ley es la que a día de hoy no tenemos es el tipo de ley que necesitamos y es la ley que nosotros

lehendakari señorías la lomce

poco tiene que ver con la caricatura de la ley que se ha hecho aquí con

que me han precedido en el uso de la palabra es la primera vez señorías que una reforma educativa se basa en evidencias en soluciones contrastadas que se han aplicado en otros países

en sus resultados eso está contrastado aquí no hemos venido a inventar nada hemos tratado de corregir deficiencias porque la educación

más eficiente de transformación social de que dispone un país

el futuro personal social y profesional de quienes participan en ella pero también determina y lo hace de una manera

la posición que un país ocupa en el mundo y señorías los países que han conseguido mejorar sus resultados educativos

educativo lo han hecho a través de modificaciones legales en las que

a la diversidad de capacidades del alumno en las que se ofrece una atención más individualizada una flexibilidad mayor de las trayectorias en las que se incrementa

de la exigencia y se propicia y valora el esfuerzo a través de la realización de evaluaciones y todo ello con un profesorado

con centros educativos que gocen de autonomía suficiente para especializarse y ofrecer a los estudiantes una oferta educativa más amplia y

que nosotros debemos hablando en serio reconocer aquí que nuestro sistema cuenta con evidentes

pero no reconocer sus debilidades sus desequilibrios no reconocer que hay cosas que no funcionan bien que en determinados aspectos

excesivamente uniforme y que no proporciona los resultados deseados y eso yo creo que es algo en lo que coincidimos todos supondría engañarnos

no dar la vuelta a nuestro sistema a nuestra arquitectura educativa como se fuese

pretende reformarla en los aspectos en los que de manera contrastada se han detectado deficiencias de ciento cincuenta y siete artículos de la loe se tocan cincuenta y siete un tercio

que no modifica la arquitectura de la educación en españa que trata de mejorarla de corregirla con tres objetivos transversales

primero aumentar la calidad de la enseñanza segundo disminuir la tasa de abandono escolar el fracaso escolar y tercero mejorar de forma significativa

para el empleo sí queremos una educación para el empleo se trata de garantizar el derecho a la educación asegurando la permanencia del estudiante en el itinerario elegido dotándole de herramientas suficientes para hacer posible su desarrollo personal y profesional

se trata también de dar flexibilidad y transitabilidad al sistema educativo y eso es lo que pretendemos adelantando la posibilidad de elegir adelantando la posibilidad de elegir la trayectoria a partir de tercero de la eso a los quince años

no que no elijan a los quince años que eso segrega es enormemente segregador por qué por qué es segregador

permiten elegir entre la formación académica y la formación profesional antes de los dieciséis años por qué aquí es segregador en francia

qué raros estos franceses que eligen a los quince como propone el partido popular y aquello funciona mejor serán raros en gran bretaña eligen a los catorce años a los catorce pero serán hijos de las gran

segregadores estos tíos que permiten elegir a los catorce

pueden elegir a los trece años y encima con buenos resultados pero

lo de alemania que pueden elegir a los trece y qué me dicen de austria austria allí la elección del itinerario se produce

en austria permiten elegir el itinerario a los diez años

hay que echarlos de la unión europea porque ellos segregan a los diez años señorías

las falsedades a un lado no traten de engañar a la gente

reversible de trayectorias un conjunto flexible y reversible en las trayectorias pero no las impone

no se impone ninguna trayectoria se permite elegir y eso es bueno contempla medidas de atención personalizada

de detección precoz de las dificultades de aprendizaje en tercero de primaria y también programas de mejora del aprendizaje anteriores a los que en la legislación actual se establece

y también contempla planes de actuación para el desarrollo de altas capacidades intelectuales y hablamos de calidad pero también queremos hablar de equidad y se ha hablado aquí de equidad en las intervenciones anteriores

y no aceptamos desde el partido popular no aceptamos ninguna superioridad moral de la izquierda en este asunto no aceptamos ninguna superioridad moral de la izquierda calidad y equidad

nadie discute que la calidad de nuestro sistema puede y debe mejorarse esto parece que es un reto compartido

a menudo escuchamos que nuestro sistema educativo es muy equitativo es un sistema educativo diseñado por los socialistas cómo no va a ser equitativo

pero no es pero esto no es verdad o al menos

señora celaá es una parte solo es una parte de la verdad equitativo en cuanto a la garantía de la igualdad de oportunidades en el acceso puede

en cuanto a la garantía de la permanencia y a la progresión de los estudiantes en el sistema en función de su situación socioeconómica por ejemplo

el abandono escolar que es del veinticinco por ciento en españa

en función de la renta familiar de los alumnos y esto hay que decirlo entre las familias que se encuentran en los niveles de menor renta el abandono escolar es del treinta y cinco por ciento treinta y cinco por ciento en cambio

en los niveles de datos de mayor renta el abandono escolar es del diez por ciento

este no es un sistema equitativo en estos términos otro dato importante hoy importante en este tiempo entre las familias que manifiestan que declaran que viven una situación desahogada entre las familias que dicen que no tienen problemas para llegar a fin de mes y viven una situación desahogada

y saben señorías cuánto es el fracaso escolar entre las familias que manifiestan dificultades para llegar a fin de mes del cuarenta y cinco por ciento

siete por ciento cuarenta y cinco por ciento de fracaso escolar esas son las diferencias esto es lo que en mi opinión

con estos datos no creen que queda mucho por hacer nosotros sí no hay nada que cambiar nosotros pensamos que sí que hay muchas cosas que cambiar tampoco un sistema educativo es

porque sus resultados sean más homogéneos no no es verdad o porque lo sean bastante homogéneos no es verdad la homogeneidad de los resultados solo

muy altos si fueran muy positivos pero no cuando además son mediocres los resultados

no hay equidad en la homogeneidad cuando los resultados son mediocres porque

a uno de cada cuatro alumnos y tampoco resuelve peor agudiza enormemente los problemas de los más capacitados

más bien al contrario para el partido popular la equidad tiene que ver con dar a cada uno lo que precisa en función de sus condiciones personales

a cada uno en función de sus capacidades de su talento y también de sus intereses

igualdad de oportunidades con igualdad de resultados no debemos confundir eso y queremos también hablar aquí hoy de la formación profesional el partido popular

la fp y saben por qué a algunos les parece que elegir a los quince años es segregar porque al parecer

quedas segregado porque para la izquierda la formación profesional debe ser algo como de segundo nivel en nuestro país algo que no se ha preocupado en prestigiar su modelo el modelo nuestro modelo educativo

crédito social a la formación profesional han hecho que en nuestra sociedad

la fp porque es verdad y necesaria y se hagan grandes discursos pero en el fondo

la fp para los hijos del vecino no para nuestros hijos creo que también en este caso hay muchas cosas que mejorar hay muchas cosas que cambiar vamos a darle a la formación profesional

que debe tener garantizando pasarelas eliminando rigideces en el tratamiento de estos

la formación profesional dual en régimen de alternancia entre el centro educativo y la empresa para favorecer

queremos hablar también de la configuración del currículum

tres bloques de asignaturas las troncales

las específicas en las que se permitirá mayor autonomía a la hora de fijar horarios y contenidos

para las cuales tanto las comunidades autónomas como los centros educativos dispondrán de mayor autonomía para ofrecer asignaturas de diseño propio que hasta ahora

es mentira lo de la recentralización con este planteamiento en tres bloques

para un diseño propio en unas cuantas asignaturas es falso hablar de recentralización de competencias

eso es lo que está haciendo se pretende ser escrupulosamente respetuoso con las competencias de las comunidades autónomas pero se trata así de distribuir las competencias de manera acorde a nuestra constitución y que cada uno asuma también su responsabilidad también el estado la responsabilidad que le corresponde

nuevos enfoques en cuanto a la enseñanza por competencias sobre todo en lo que se refiere a las básicas la comunicación lingüística las competencias científicas técnicas y matemáticas

necesitamos mejorar el conocimiento de las lenguas extranjeras porque en nuestro país se dedican ingentes recursos

se obtienen resultados muy pobres el estudio europeo de la competencia lingüística del dos mil doce

el décimo entre catorce países nuestro país

mayor esfuerzo económico hace en educación y también

es un instrumento para la innovación para las nuevas tecnologías

la competitividad de los jóvenes en un mundo interconectado y propone también ganar en trasparencia autonomía de los centros sí

y esta ley va a permitir una mayor autonomía de los centros pero autonomía de los centros sí pero también con rendición de cuentas

autonomía sí pero con responsabilidad responsabilidad de los resultados un sistema

un sistema que no tenga miedo a la evaluación un sistema en la que se fije la señalización del aprendizaje en las diferentes etapas con evaluaciones de diagnóstico y finales como mecanismo de mejora eso es

partes importantes de la lomce un sistema educativo respetuosa con la diversidad

pero que sea coherente esta es una ley para el conjunto de españa no es una ley para el chiringuito de cada uno ni para defender intereses particulares de ningún sector esta es una ley para defender el interés general de españa esta es una ley para dar coherencia

de la educación en españa respetuoso con la capacidad de las comunidades autónomas con la diversidad de nuestro país pero queremos diecisiete sistemas contradictorios y contrapuestos queremos una educación interconectada cooperativa

que sume y no que reste queremos una educación vasca aquí abierta

qué miedo hay a eso qué miedo hay a dar coherencia

a tener evaluaciones externas por qué tienen miedo a pruebas externas que no se fabriquen diseñen y se corrijan aquí

que no fabriquen diseñen y corrigen ustedes por qué por qué tienen miedo a eso señorías la lomce es necesaria no podemos pretender

que los resultados cambien si no

serias no podemos pretender que nada cambie si mantenemos el mismo marco normativo si hacemos lo mismo pretender

de cada cuatro alumnos españoles no parece lo propio de un país que se preocupa por la igualdad de los ciudadanos que quiere basar su desarrollo en el conocimiento y en el crecimiento inteligente nosotros defendemos esta ley porque es una ley

nosotros no queremos entrar en debates estériles ha habido debates muy importantes en las cortes generales en relación con esta ley no se ha hecho

de peso contrastadas en relación con sus críticas esta es una ley que mira al futuro esta es una ley que tiene largo recorrido porque además no hay un proyecto alternativo

y realizan críticas absolutamente contradictorias tratamos de mirar a europa a aquellos países que están en este momento obteniendo

corregir los desequilibrios de nuestro sistema esta ley sale respaldada con una mayoría de españoles con una mayoría de las cortes generales con ciento ochenta y dos diputados de los trescientos cincuenta

la loe salió respaldada con ciento ochenta y uno tienen menos legitimidad

respaldada por una mayoría absoluta de españoles esta ley tiene legitimidad saben por qué porque los españoles la mayoría de esta sociedad la ciudadanía las familias los padres las madres

mejor educación para sus hijos y saben que hay muchas cosas que mejorar en nuestro sistema educativo y nosotros sabemos

ese respaldo el respaldo de las madres y padres que quieren la mejor educación para sus hijos que nuestro sistema educativo forme a sus hijos

los mejores instrumentos las mejores herramientas para poder competir el día del mañana para favorecer el empleo de sus hijos

para favorecer también su desarrollo personal y su desarrollo laboral en españa y en europa en cualquier país aquí si quieren trabajar aquí

nosotros defendemos esta ley porque es una ley que mira como les decía al futuro y porque

en este momento es la ley que nuestro país necesita para corregir todas las desigualdades de las que les hablo es una ley además que creo que tendrá

y lo único necesario es que se ponga en marcha cuanto antes que ustedes no impidan

es que esta ley se implante cuanto antes y pueda demostrar también

que esta ley la implicación de todos sus planteamientos la implementación en el sistema educativo de estos planteamientos traerán

onenean ere lau urte galduak izango dira señorías los preámbulos de las leyes no son inocentes

más tarde maquillado decía la educación es el motor que promueve la competitividad de la economía esta filosofía precisamente

son los supuestos talentos naturales diferentes de un estudiante a otro los que parecen marcar el deslinde

con opciones divergentes un modelo ramificado que separa a los alumnos mediante un sistema de pruebas externas en vías cada vez más diferentes y difícilmente reversibles

dibuja un modelo de tronco único con una diversidad de vías internas de valor equivalente y caminos de ida y vuelta entre la formación y la vida activa frente a la inclusión la cohesión social y el ejercicio de la ciudadanía democrática de la loe la lomce

una concepción de la educación determinista

de ese valor de la educación como transformadora de las condiciones sociales y económicas de las personas de su capacidad para promover su enriquecimiento personal

lo que las aboca a no mejorar itinerarios según los talentos centros que seleccionan a su alumnado

un diseño que pone en cuestión el éxito del modelo educativo del país en relación con la equidad un valor precisamente muy altamente apreciado por pisa

obtiene mejores resultados que en otros países hemos efectivamente de mejorar los niveles de excelencia

que la educación es el mejor salvavidas de la economía los sabemos casi todos casi todos

excepto aquellos gobiernos que promueven recorte sin límite

en educación en casi dos puntos en términos del pib

que la educación es algo más que todo eso es lo que no parece interesarle

pero la educación es eje de todo cambio personal y social deslinde

motor de igualdad y además puerta a la economía por lo que es deber de los poderes públicos en consecuencia asistir a ese derecho fundamental de la educación de todos

para impulsar el talento global y mejorar la competitividad de todo el país para cambiar precisamente nuestro modelo productivo obsoleto por otro sustentado en actividades intensivas en conocimiento para ello hemos de trabajar mucho más en inversión educativa recortes en más becas en más igualdad en el acceso y para eso es preciso seguir trabajando

que sustente el conocimiento con una universidad bien tratada y una investigación y desarrollo capaz de transferir valor añadido al mundo productivo sin embargo recortes y lomce son parte de un mismo plan más aun

blinda los recortes en educación más allá de la coyuntura de la crisis para el presente y para el futuro

low cost en el que los estudiantes más vulnerables

y crece la desigualdad y esta es justamente nuestra máxima preocupación la de cerrar las puertas bien por falta de recursos o por dificultades en el aprendizaje a las personas más débiles del sistema no es verdad que con más selección se mejore la educación

produzca mejores resultados no queremos de ninguna manera una educación reproductora de las desigualdades sociales el valor de la equidad en el sistema educativo

es nuestra máxima fortaleza y calidad y equidad o equidad y calidad

nace precisamente de la voluntad de la derecha española de imponer su modelo excluyente y solitario en la educación

esta es la superioridad moral por gobiernos socialistas esta ley

ampara la regresión en inversión educativa con un retroceso sin precedentes en los servicios necesarios para la escolarización de la que dependen miles de familias en españa

combinado con una reducción drástica de profesores se traduce en un retroceso importante justamente de los elementos esenciales de la calidad de un sistema educativo así

se traslada a la organización y a los fines de la educación cuando ni la sociedad nos demanda un cambio de modelo sino su mejora

recomiendan cambios estructurales sino acciones y políticas de mejora la lucha contra la exclusión de una buena parte de la sociedad española propiciada por las altas tasas de abandono escolar temprano y por los bajos niveles de calidad que hoy reporta el sistema educativo dice la lomce que es su principal impulso pero los datos no le siguen

su abandono escolar temprano desde el dos mil seis al dos mil doce

al nueve tiempo en el que precisamente alemania que junto a liechtenstein que es el único país que segrega a los once empeoró en un punto ese

además con esta misma legislación educativa básica observamos unas diferencias más que notables entre el sistema educativo vasco y la media española luego se puede

son tan grandes las diferencias entre el sistema educativo vasco y la media española como entre finlandia y españa la media de españa por lo que no

que viene progresando adecuadamente si bien con los cuarenta

de franquismo a la espalda la causante de los males del sistema entran otros factores entre ellos las características del sistema productivo español y la cultura media de la sociedad española que tiene especial incidencia pero el pp

interesadamente catastrofista en la mejor coartada para dictar su ley sin corresponderse con la realidad de los hechos

de simplificación del currículum el refuerzo de los conocimientos instrumentales la flexibilización de las trayectorias el desarrollo de sistemas de evaluación externas incrementos de las transparencias de los resultados formación de la autonomía de los centros veamos qué hace con todo ello qué hace con la simplificación curricular introducir un currículum que es

grupo por cierto al que relega la lengua y literatura vasca y en suma una complejidad imposible de administrar

confunde además el principio de flexibilización de trayectorias con la segregación temprana tercera

y la clasificación del alumno haciendo en la práctica totalmente inviables los cambios de trayectoria que son connaturales a la adolescencia señor oyarzabal no los puede hacer salvo pasando

el sistema educativo vasco lleva realizando pruebas censales externas desde el año dos mil nueve utilizando los resultados y analizándolos junto a las comunidades educativas para establecer planes de mejora no es ninguna novedad para nosotros esa transparencia

rankings de centros en cuanto a la autonomía de los centros

desde la ley de la escuela pública dos mil tres tenemos autonomía de los centros que vamos implementando con el tiempo y qué nos dice la lomce para la autonomía de los centros pues oiga pérdida de autonomía de los centros porque ni los consejos escolares

ninguna capacidad más allá de la consultiva ni los directores de los centros van a ser

pérdida de autonomía el sistema educativo vasco

de cómo con la actual normativa básica se pueden tener indicadores equivalentes a los europeos en qué en la tasa de abandono escolar en la tasa de repeticiones

nosotros lo hemos logrado y en la misma legislación básica

tres ámbitos sobre los que hacer especial incidencia

las lenguas y la modernización de la formación profesional pero más allá de mencionarlas

no hace nada más por lo tanto la distancia entre lo enunciado y la realidad

es palmaria y en cuanto a formación profesional se refiere qué quiere que le diga señor oyarzabal

es la de convertirla en una opción de descarte para el alumnado que no está en condiciones de cursar el bachillerato así es eso dice la ley o

vías de las aplicadas no de las académicas de las aplicadas

todos los contenidos del proyecto van en consecuencia en dirección contraria a los principios que dicen inspirarlo

nos apartamos y esta es otra de nuestras máximas preocupaciones de la estrategia europea dos mil veinte

externas e itinerarios tempranos en plena adolescencia del alumno separándonos justamente de lo que hace europa y los países más avanzados sabe usted lo que dice la ocde la ocde ha llegado a demostrar que la selección temprana fíjese usted la ocde

ejerce un efecto negativo en los alumnos asignados a niveles más bajos y aumentan las inequidades sin elevar rendimiento promedio

por qué no nos ha dicho usted que finlandia separa a los dieciséis años

que noruega hace lo mismo oiga nuestro ejemplo en todo caso

porque mire usted que para graduarse en eso se tenga que superar una evaluación final con pruebas diferentes en función de la opción que vaya a tomar el alumnado bachillerato formación profesional es decir doble titulación es cortar la comprensividad hasta los dieciséis años

a los propios alumnos y primar una diferente titulación que vulnera el principio de igualdad de oportunidades

a un papel secundario y nos devuelve a los años setenta

que una primera elección en tercero de la eso vaya

la segregación temprana eleva el fracaso escolar y las reválidas abonan el abandono escolar ustedes van a ir en dirección contraria a lo que dicen pretender y qué podemos decir del tratamiento de la religión como materia alternativa o asignatura espejo con valor académico

en fin esto sí que nos devuelve al ministro otero novas en mil novecientos ochenta verdad el derecho de unos a cursar religión

por lo tanto esta ley aquí se pone al servicio de los sectores más conservadores de la jerarquíade la iglesia católica ya no sé si tanto de la actual porque a lo mejor el papa francisco es el que primero cambia esto esto

a la eliminación de la educación para la ciudadanía en contra de las numerosas recomendaciones del consejo de europa y de la unión europea implica discriminación

que no pueden hacer educación en valores por lo visto como para los que no la cursan y en esto ha de tomar debida cuenta también el gobierno vasco que ya ha avanzado la oferta de religión y de la alternativa para el bachillerato superando aquí incluso las intenciones de la propia lomce además la

ha de ser considerada también por el gobierno vasco con la debida cautela siguiendo en este punto las recomendaciones también que hace además el consejo de estado para que estos proyectos de estos centros vayan progresivamente avanzando hacia un proyecto mixto

la educación pública a la educación concertada al introducir la demanda social como criterio de planificación uniéndola al reconocimiento explícito

no pueda suponer desventaja alguna y a la posibilidad de ceder suelo público a los centros privados implica toda una subordinación de la red pública a la red privada que altera poderosamente la obligación de los poderes públicos con respecto a la educación pública y que desde luego no está prevista en la constitución además la libertad de elección de centro

en lo que va a ser que los centros elijan a los alumnos por lo tanto esto rompe el principio de igualdad y ya desde una perspectiva competencial y muy importante

de modelo contrario al espíritu constitucional supone pasar del modelo tradicional de competencias compartidas y articuladas a tres niveles

comunidad centro educativo una competencia que podríamos denominar horizontal

donde el estado fija absolutamente el contenido del horario mínimo y los criterios de evaluación de las asignaturas troncales hasta el punto que puede llegar a impedir de facto que las comunidades autónomas desarrollen políticas propias en materia educativa

la competencia que otorga la norma al gobierno para determinar el horario mínimo de las materias troncales que no será inferior al cincuenta por ciento nos deja en una ostentoria ostensible inseguridad jurídica

se reserva para sí el gobierno de la administración general del estado se reserva para sí determinar los estándares de aprendizaje evaluables

al bloque de asignaturas específicas se reserva para sí en competencia exclusiva del estado la regulación de las condiciones de obtención expedición y homologación de títulos académicos y las evaluaciones del final de etapa

y además las bases para la utilización y el acceso público a los resultados de las evaluaciones con todo ello señorías la autonomía la autonomía de la comunidad y la autonomía de centros queda seriamente tocada por todas esas razones anteriormente expuestas asistimos a una devaluación del rango además de la lengua que corresponde a la lengua oficial

quiero ir concluyendo ya con una mención especial a la desaparición en la ley de la consideración de la ley de la educación como servicio público esencial una cuestión importante con el riesgo que esta definición esta ausencia de servicio público esencial conlleva al sistema educativo

porque sitúa a todos los agentes en el mismo nivel de responsabilidad

a través de sus centros públicos fundamentalmente los principales garantes de la prestación de dichos servicio en condiciones de igualdad con todo el respeto a la oferta

y todo ello resulta tremendamente preocupante todo ello resulta tremendamente preocupante porque qué duda cabe que estas medidas van a permitir

y en la consideración de la educación como una mercancía sometida a las leyes del mercado y esto atenta gravemente contra el derecho de todos y todas a una educación de calidad

que desean para sus hijos así que

va a tener un grave impacto en el sistema educativo vasco porque rompe

y que en el caso vasco han constituido han venido constituyendo una base muy importante de estabilidad y de acuerdo

en el tratamiento de las lenguas oficiales en el impulso a la educación infantil y en su valoración como etapa asistencial en la formación profesional considerada como carril de segunda en el ejercicio de competencias en el tratamiento de la religión en la desaparición de la educación para la ciudadanía

en la planificación escolar en la consideración social de la educación y entonces y en la valoración de la educación pública

qué hacer esa es la pregunta qué hacer en primer lugar requerimos una respuesta de firmeza por parte de este gobierno

de menos pero hemos de trabajar dentro del marco de la ley un gobierno se debe al principio de legalidad pero hemos de trabajar

nuestro sistema nuestras competencias con inteligencia evidentemente es preciso mantener nuestras características propias

y recurrir ante los tribunales todas y cada una de las competencias que se vean vulneradas afortunadamente se lo digo además con aprecio esta ley señor oyarzabal no va a durar mucho apenas

a que pueda entrar en vigor nuestra comunidad tiene que exigir exigir con firmeza con claridad con discurso público disponer del tiempo necesario para desarrollar

un decreto por ejemplo tarda ocho meses solo en tramitarse este parlamento respalda la derogación comprometida es una de las propuestas que hemos hecho nosotros con los grupos de la oposición

e insta al gobierno vasco a presentar recurso ante en tribunal constitucional en su caso la suspensión cautelar no da mucho tiempo con claridad con firmeza con decisión

a pie de cañón trabajando por la educación porque la educación es eje y fundamento de todo progreso desde el desarrollo personal

y desde luego trabajando para que cuanto antes la educación vasca pueda retomar y recuperar la senda de la apertura y la modernización

al progreso social personal y como comunidad nada más y muchas gracias eskerrik asko

para la mejora de la calidad educativa izenburu

izena eta izana ez datoz bat hay alguien en contra del título de la ley no nadie el título y el objetivo

intachables el problema es que el título de la ley y el contenido no tienen nada que ver esa ley nunca podrá mejorar nada ni la calidad

mala en sí pero como hemos dicho hasta la saciedad en nuestro caso en lo que respecta a euskadi es doblemente mala porque no supone mejora alguna para nuestro sistema hace once meses y en esta

nuestro grupo planteaba algunas preguntas que entiendo que a día de hoy siguen sin responderse en qué se ha basado el ministerio para proponer esta ley

dato o evidencia señor oyarzabal usted por las manifestaciones que ha hecho aquí debe ser el único privilegiado de poseer esa información

maquillar los malos resultados del estado español y mejorar las estadísticas han pasado muchos meses desde que pedimos un análisis riguroso exhaustivo y honesto que justificase de modo fehaciente la necesidad la idoneidad y la oportunidad de los cambios que se estaban proponiendo

a esa solicitud entonces ya dijimos que el partido nacionalista vasco no aceptaría ningún cambio cuya necesidad no estuviera avalada con datos relativos

educativos que no aceptaríamos que una ley no tuviese en cuenta nuestras singularidades características nuestra evolución nuestros resultados y nuestros retos de futuro

nuestra realidad nuestros datos no tienen nada que ver con lo de otras comunidades en gran medida ya hemos alcanzado los indicadores que la lomce establece como objetivos para el conjunto del estado

tenemos una alta satisfacción de las empresas en relación a la formación profesional

como proyecto recentralizador y uniformizador que es no tiene en cuenta

comunidades autónomas que son extremadamente diferentes nunca hemos negado que todos los sistemas educativos tienen margen de mejora también el nuestro

hobekuntza lortze aldera gurean behintzat hala izan da pero las medidas tienen que ser otras señor oyarzabal tienen que ser medidas pensadas

y sobre todo consensuadas con la comunidad educativa creemos que hay margen de mejora en todo el sistema y en cuanto a las competencias que el alumnado debe adquirir

pero también estamos convencidos de que esta ley no nos sirve para nada al menos para nada bueno el partido nacionalista vasco aboga por una

mediante unos modelos de aprendizaje acordes con el siglo veintiuno mediante la transparencia de datos mayor profesionalización de docentes directores y la autonomía de centros consolidando un modelo que mire a europa y sea compatible con los sistemas educativos europeos más avanzados

son muchos los aspectos de la lomce que nos preocupan tantos que

pero hay determinadas cuestiones que queremos traer a este debate porque entendemos que se han superado las líneas rojas más elementales

presenta una visión empobrecida de la educación priorizando la empleabilidad al desarrollo personal

unas bases sólidas para el desarrollo equilibrado de la persona a lo largo de su vida en todas sus dimensiones entendemos que la lomce presenta una visión equivocada de la calidad educativa

exclusivamente en términos de mejora de los resultados académicos del alumnado de las principales características que identifican a un sistema educativo de calidad es la equidad

en la trayectoria y en los resultados otra cuestión que nos preocupa mucho

no hay una intencionalidad clara de superar el paradigma académico

por el competencial lo que respecta al ámbito competencial entendemos que el respeto

la especialidad o singularidad de la competencia de euskadi en materia educativa cuyo ejercicio se ha plasmado entre otras en la ley de la escuela pública vasca que en su exposición de motivos recalca este origen singular de las competencias de euskadi en materia educativa a lo que cabría añadir

considerar como es la existencia de dos lenguas oficiales

al no reconocer a la comunidad autónoma vasca especialidad alguna en materia de enseñanza desconoce su singularidad

y que encuentra amparo y respeto en la disposición adicional primera de la constitución en definitiva entendemos que vulnera el régimen competencial transgrede el bloque de constitucionalidad y que es un claro intento de recentralización

obvia que ha sido precisamente en el ejercicio del autogobierno en la aplicación de los principios de pluralidad

enraizamiento social y cultural y participación en la totalidad del sistema educativo vasco lo que ha posibilitado construir con un amplio consenso entre los diversos agentes

padres y madres escuela pública y concertada e instituciones en definitiva un modelo estable basado en la mejora continua y la excelencia

la definición de los contenidos de las enseñanzas y la evaluación por lo que se refiere a la definición del contenido de las enseñanzas estándares de aprendizaje y criterios de evaluación la determinación de los contenidos comunes se transforma en una regulación homogeneizadora que no responde

sino que implica la transición desde un sistema en el que la regla de mínimos marcaba el contenido de la formación común que debía ser impartida en todo el alumnado a otro sistema

la capacidad normativa de euskadi no queda debidamente garantizada a través de su posibilidad de intervención en la definición residual del bloque de asignaturas troncales y en la determinación del contenido de los bloques de asignaturas específicas y de libre configuración una intervención autonómica que por imperativo del artículo dieciséis del estatuto no puede ser subsidiaria

únicamente a la determinación del contenido de materias que aunque importantes en sí misma debieran irrelevantes en la obtención de los correspondientes títulos académicos

que el estado se reserva casi en su totalidad gure taldearentzat ez da onargarria lomcen planteatzen den ebaluazio sistema sistema aztertuta

pública feroz y directa entre centros docentes es decir centros que obtienen buenas calificaciones y centros con calificaciones no tan buenas

homogéneas para todo el estado e individualizadas que condicionarían claramente

y por lo tanto invadirían competencias ajenas porque esa labor corresponde desarrollarla las comunidades autónomas y a los centros educativos el sistema de evaluación centra al alumnado y al profesorado en una prueba final que va a eclipsar en gran medida los diferentes planteamientos existentes

y centrada en las competencias como aglutinante del conocimiento las capacidades las actitudes y aptitudes para evolucionar como personas y aportar valor a la sociedad

ya que el sistema vasco de formación profesional tiene absolutamente superado el planteamiento de la lomce señor oyarzabal el adelanto de itinerarios en países europeos

entre los diferentes itinerarios y eso hace que un modelo educativo sea flexible y adaptable a las necesidades del alumnado

y sus itinerarios son cerrados creemos en la formación profesional y no aceptamos

la fp tiene que estar obligatoriamente en la primera división

tiene que trabajar la innovación aplicada tiene que crear empresas generar emprendizaje tiene que trabajar otro tipo de metodologías en euskadi tenemos un sistema desarrollado

un sistema con altos parámetros de cualificación profesional y alto grado de demanda y empleabilidad es por ello que no vamos a aceptar que se dé ningún paso atrás y se pretenda alejar al sistema del tejido industrial y empresarial vasco

hay una cuestión que en cierto modo aglutina o engloba todas las críticas posibles a la lomce

la absoluta falta de consenso en cada una de las cuestiones reguladas en el articulado de la ley es una ley sin el más mínimo consenso de la comunidad educativa

una ley que nace sin consenso de los partidos políticos con el único apoyo del partido popular una ley rodillo a pesar de cientos de enmiendas presentadas

como en el senado durante todos estos meses se han aceptado poquísimas y todas ellas de escasa importancia desde el punto de vista educativo y con muy poco peso político

del suficiente consenso social y político necesario para garantizar la estabilidad del sistema educativo el sistema educativo vasco necesita un acuerdo político y social de base para evitar tanta inestabilidad y falta de continuidad y así poder consolidar la mejora pero esta ley no parece sostenible en el tiempo ya que su éxito se medirá únicamente por los resultados del alumnado sin tener en cuenta

además tanto la experiencia como las investigaciones sobre el cambio aseguran que el cambio se produce cuando los individuos y los grupos se implican de forma voluntaria y consciente y se asegura la participación de todos y todas no cuando se les impone el cambio tal como esta ocurriendo con las lomce el desacuerdo del partido nacionalista vasco con la lomce

para derogar la reforma educativa y trabajar juntos por una nueva ley educativa que cuente con el máximo consenso al igual que el partido nacionalista vasco el gobierno vasco con el lehendakari urkullu a la cabeza ha mostrado su disconformidad con la ley desde un inicio

y desde entonces ha tratado de mantener una relación directa con el ministerio para conocer las posibilidades de diálogo y de acuerdo y de negociación bilateral

con responsabilidad porque eso es lo que le corresponde a un gobierno tratar de llegar a acuerdos con terceros cuando sus intereses están en riesgo pero la voluntad

también con su actitud no ha dejado otro remedio que estar en contra acaso creía que este proceso podía terminar de alguna otra manera

la preocupación y el rechazo eran tales que la oposición forzó la convocatoria de la comisión general de las comunidades autónomas para

de la reforma educativa en la que podían participar con voz pero sin voto los gobiernos autonómicos el gobierno vasco no desaprovechó esa oportunidad y a finales del mes de octubre la consejera uriarte intervino

para mostrar la absoluta disconformidad del gobierno vasco con el proyecto de ley jaurlaritzak hasieratik esan zuen bere esku zeuden tresna guztiak

arriskuan edo zalantzan jarriko a diferencia del gobierno estatal el gobierno vasco se ha marcado unos objetivos que constituyen

y de nuestro entorno preservar y mejorar los niveles de calidad de la educación vasca hacia la excelencia

válida para demostrar que somos capaces de desarrollar potencialidades de nuestro sistema teniendo en cuenta

y actuando con respeto a nuestro marco competencial vigente por lo tanto consideramos que es una iniciativa válida

elaborar y consensuar el marco del modelo educativo pedagógico propio elaborar y consensuar los decretos por los que se establecen los currículos

tres iniciativas encadenadas y complementarias que nos pueden servir para labrar un camino hacia la mejora continua de la totalidad de nuestro sistema educativo vasco

una ley que garantice la estabilidad al margen de cambios políticos una ley que permita que se hagan mejoras continuas una ley que garantice la autonomía de los centros una ley consensuada con los agentes educativos y con los partidos políticos para que sea una ley eficiente y con futuro

disparates que solo logran el consenso del proponente consigo mismo y el partido nacionalista vasco no está dispuesto a eso no queremos propuestas ni leyes sin consenso es por ello que proponemos avanzar sin prisa pero sin pausa trabajar codo con codo con los agentes educativos sociales y políticos para llegar a consensos y acuerdos esa es una de las grandes diferencias entre el gobierno vasco y el

a pesar de tener un sistema de calidad buenos resultados aspiramos a avanzar y a mejorar y las propuestas de avance de mejora se trabajan y consensuan con la comunidad educativa no se imponen ya le gustaría al señor wert tener el consenso que tiene

acuerdo calidad y estabilidad tres pilares sobre los que hemos construido y sobre los que construiremos la mejora de nuestro sistema educativo

de mayorías absolutas y de otras dificultades no tenemos ninguna duda de que el gobierno vasco continuará trabajando y utilizando todos los resortes legales o de cualquier otro tipo que estén a su alcance para preservar la calidad y el buen nivel del sistema educativo vasco un sistema educativo vasco que tiene su pilar fundamental en el pacto entre diferentes

de que los agentes educativos seguirán trabajando y colaborando con las instituciones como lo han hecho hasta ahora para seguir avanzando desde el pacto entre diferentes eskerrik asko

lamentando sinceramente que en una cuestión tan capital para una sociedad como es la educación nos encontremos con un escenario que en lo que a euskadi se refiere nos ofrece el siguiente diagnóstico

no respeta las competencias de naturaleza histórica de la comunidad autónoma de euskadi en materia de educación

pedagógica organizativa y económicamente carece del necesario consenso social y político que garantice la estabilidad del sistema educativo

rompe además el actual consenso sobre la finalidad de la educación básica cual es asegurar una base sólida para el desarrollo equilibrado de la persona a lo largo de su vida en todas sus dimensiones

no atiende a nuestras necesidades de mejora nos coloca en un escenario de regresión ante el camino recorrido los últimos veinte años

en nuestro sistema educativo plantea unos objetivos para justificar su implantación ya superados en el caso del sistema educativo vasco responde más a un intento de centralización y uniformización de los sistemas educativos del estado

atender a las necesidades reales de cada comunidad autónoma sarrera labur honen ondoren

eta euren gaitzespena azaldu zuten desde ese primer encuentro nos pusimos a trabajar para defender nuestro sistema educativo sin escatimar ninguno de los recursos disponibles en nuestras manos y allí se nos ofrecían dos escenarios posibles rechazar públicamente ese proyecto de ley y quedarnos a la espera de su aprobación con los brazos cruzado

o rechazar con contundencia el proyecto de ley y seguir peleando seguir discutiendo sobre sus contenidos y como saben elegimos la segunda opción

esta segunda posibilidad no porque creyéramos que conseguiríamos convencer al ministro wert ni porque pecáramos de ingenuos

hemos escuchado tomamos esa decisión simplemente por responsabilidad

dialogando no significa claudicar ceder sino todo lo contrario el gobierno vasco no puede levantarse de una mesa y abandonar la reunión mientras se deciden asuntos

esto es lo que conlleva el ejercicio de responsabilidad que como gobierno nos corresponde hemos actuado con responsabilidad

con hechos y trabajo no solo declaraciones utilizando en cada momento todas las medidas legales

son múltiples las reuniones valoraciones conjuntas negociaciones en distintas mesas en el congreso en el senado que se han ido realizando con el objeto de modificar la ley de ejercer nuestras competencias y preservar nuestro sistema educativo y es en esa línea en la que pensamos seguir trabajando

ya en enero solicitamos formalmente la necesidad de mantener encuentros bilaterales con el ministerio de educación y cultura

es compartida por una mayoría de esta sociedad la de la negociación bilateral eusko jaurlaritzak alde bitariko harremanak landu beharra dauka

fue el ministro quien cerró la puerta del diálogo y de una posible negociación bilateral

más tarde exigimos una moratoria para que se pudiera trabajar en el consenso aprovechando que en aquel momento estábamos ante un borrador de un anteproyecto de ley y la respuesta fue la misma desde ese instante las negociaciones cambiaron de escenario

nuestra voluntad por lo tanto es impedir que la lomce cercene nuestro modelo educativo cuya eficacia ha quedado patentemente mostrada

en materia de educación reconocidos en el estatuto de autonomía tomando como base la experiencia acumulada por el sistema educativo

el programa de gobierno y los objetivos estratégicos establecidos en el marco para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación dos mil veinte el gobierno junto con la comunidad educativa

dos mil veinte tratará de consolidar un sistema educativo vasco

mediante propuestas dotadas de viabilidad y seguridad jurídica de hecho nos hayamos trabajando ya desde hace unos meses en este sentido con los agentes educativos

a diferencia de otras comunidades autónomas además de mostrar nuestro más absoluto rechazo

también trabajamos en desarrollar nuestro propio sistema nuestra normativa a efectos de avanzar en un camino hacia la excelencia todo ello de la mano de los agentes de la comunidad educativa

que nos permiten desde la seguridad jurídica un desarrollo reglamentario propio se trata de preservar estas competencias

defendemos un sistema sólido y riguroso a salvo de cambios políticos coyunturales flexible y solidario que garantice la igualdad de oportunidades para todo el alumnado la política educativa con la que trabajamos se basa en la construcción de un sistema anclado en los valores el modelo educativo impulsará la convivencia la conciliación la solidaridad la igualdad de oportunidades la tolerancia el esfuerzo la corresponsabilidad y el bienestar de la ciudadanía el gobierno vasco ha querido contar con el conocimiento

a la hora de tomar posición hemos compartido análisis

y ese apoyo y ese impulso es fundamental para un gobierno que pretende representarles a todos ellos en este pulso que debiera ser únicamente educativo pero que

y es lo que estamos haciendo estamos liderando el rechazo a un proyecto de ley cargado de peso ideológico con un indisimulado afán centralizador con una larga lista de objetivos ocultos que no darán satisfacción ni siquiera a quienes dicen estar contentos

desde luego a nosotros no y por una larga lista de motivos

como último paso el pasado mes convocamos incluso la comisión general de las comunidades autónomas del senado

y tuve la oportunidad de poner de manifiesto ante la cámara la rotunda oposición del gobierno vasco al proyecto lomce aún así y tras su vuelta al congreso de los diputados

que se pretende si bien ha sido mejorada en algunos aspectos no obstante sigue resultando lesiva para el sistema educativo vasco

constitucional de reparto competencial por un exceso ilegítimo en el ejercicio de la competencia estatal para señalar un marco básico educativo

quedando reducidas a una mera aplicación en la mayoría de las regulaciones propuestas sin que lo expuesto suponga un desconocimiento por nuestra parte del ámbito propio de la competencia estatal

programación general de las enseñanzas y fijación de las enseñanzas mínimas

el texto del proyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa

especialidad alguna en materia de enseñanza desconoce su singularidad constitucional derivada de sus derechos históricos por otro lado

están ya superados en el caso del sistema educativo vasco nuestra gran preocupación es la mejora continua de nuestro sistema educativo un sistema con unos resultados

aunque en próximas fechas tendremos nuevos datos cito a modo de ejemplo

pues bien en euskadi según eurostat dos mil doce es de un once coma cinco por ciento la media española como bien ha dicho el señor oyarzabal es del veinticuatro coma nueve

por ciento

pues bien en euskadi es del ochenta y dos coma noventa y dos por ciento

la tasa vasca de graduación es del cincuenta y tres coma cinco por ciento y la tasa de españa un cuarenta coma ocho por ciento y para terminar a modo de ejemplo el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan

en euskadi trabajamos para bajar la tasa de un quince coma tres por ciento

a la vista de estos resultados es claro que no podemos aceptar ni aplicar modificaciones legislativas unilaterales y homogenizadoras

euskal curriculuma bi mila sei cualquier cambio general como el que se propone con la lomce

tanto pedagógica organizativa como económicamente hay que tener en cuenta que esta sería la séptima modificación de la legislación educativa en el periodo constitucional la historia interminable de las reformas educativas cada vez que hay cambio de gobierno es una constante programas renovados en mil novecientos ochenta y uno

logse mil novecientos noventa loce dos mil dos

dos mil seis y ahora la lomce en euskadi hemos sabido avanzar y construir nuestro sistema educativo de calidad valiéndonos de nuestras competencias

ari diren jakitun eta guztien parte hartzea ziurtatzen denean además tanto la experiencia como las investigaciones sobre el cambio

se implican de forma voluntaria y consciente y se asegura la participación de todos no cuando se les impone el cambio

y que la convierte en atentatoria de nuestro sistema educativo permítame que resalte algunos de los que a nuestro entender son los aspectos más lesivos

la piedra angular del planteamiento e implementación de las modificaciones de la lomce es su propuesta de evaluación

la práctica de la docencia y del desarrollo curricular la propuesta de evaluaciones finales elimina en gran medida las posibilidades de una educación individualizada centrada en competencias aglutinante de conocimiento capacidades y actitudes para evolucionar como personas y aportar valor a la sociedad

el crecimiento de la economía vasca requiere una formación profesional que asegure personas con un alto nivel de preparación y conocimiento mayor especialización y alta cualificación del alumnado

de fp indispensable pues un mayor nivel de formación de base adquiridas bien en la secundaria o bien en el bachillerato imposible

nos proponen una ley que establece un nuevo nivel de fp básica que sustituye los programas de cualificación profesional inicial

pero además para complicarlo más permiten el acceso directo de la fp básica a la fp de grado medio y posteriormente el paso directo también de la fp de grado medio

la formación profesional del país vasco está a la vanguardia de la europea una formación profesional que tiene una altísima valoración en el tejido productivo vasco

consigue dar una buena formación al alumnado con mayores problemas o más desfavorecidos y que recupera al cuarenta por ciento de dicho alumnado para que continúe por el sistema educativo hacia el título de secundaria obligatoria o hacia el título de técnico de grado medio y esto

ikasleei baino y además no podemos dejar de resaltar que el estado monopoliza todas las atribuciones

la separación temprana del alumnado en diferentes itinerarios educativos

a las recomendaciones internacionales se promueve la desregulación del funcionamiento del centro docente

los centros educativos pierden capacidad de decisión sobre los directores de los mismos a favor de la administración educativa la ley promueve un sistema educativo segregador que se contrapone al modelo vasco inclusivo e integrador basado en la igualdad de oportunidades la equidad y la calidad

a modo de resumen la lomce supondría un retroceso de más de veinte años en el desarrollo alcanzado gracias a nuestro sistema educativo en resumen

hemos mostrado una postura firme pero a su vez responsable

con el apoyo de las fuerzas políticas representadas en este parlamento a excepción del partido del gobierno español

en estos momentos con el texto definitivo y sin posibilidad de cambio

y una vez que la ley sea definitivamente refrendada el gobierno vasco

al tribunal constitucional tras la definición por los servicios jurídicos de los ámbitos susceptibles de recurso y la materialización del mismo

tras un primer análisis y a la espera del texto definitivo de la ley

que bien por suponer una injerencia en el ámbito competencial propio de la comunidad autónoma de euskadi bien por materializar un menoscabo efectivo del derecho fundamental a la educación o por violentar principios constitucionales pudieran ser cuestionables desde el ámbito que tratamos

podrá plantearse la invasión de competencias de la comunidad autónoma de euskadi en dos aspectos esenciales como son la definición de los contenidos de las enseñanzas estándares de aprendizaje y criterios de evaluación y la evaluación de los aprendizajes

y el modelo de formación profesional en relación con el principio de igualdad

es cuestionable la participación de la comunidad escolar como se recoge en los artículos ciento veintisiete ciento treinta y dos

somos conscientes de que el recurso tiene su recorrido no resuelve el problema de forma inmediata ya que aunque la ley esté recurrida

es por ello que no es la única medida que estamos adoptando para preservar nuestro sistema educativo

reiterado en otras ocasiones tras la aprobación de la ley posteriormente español tiene que establecer aprobar y publicar sus reales decretos básicos de desarrollo de la ley se analizarán dichos decretos y en su caso serán recurridos si nuevamente invaden nuestras competencias

toca el de las autonomías la comunidad autónoma del país vasco debería entonces

pero en el marco de la normativa básica el no aprobar decretos autonómicos de desarrollo no es un impedimento a la eficacia de los reglamentos básicos estatales en esta situación

luego las administraciones tienen que enviar a los centros las nuevas instrucciones y estos tienen que adecuar las plantillas espacios y equipamientos a las nuevas especialidades formar al profesorado regular los nuevos procesos de matriculación

y todo esto según el ministerio en menos de nueve meses además está el coste que supone la implantación de la nueva ley

por la puesta en marcha de este proyecto en el curso dos mil catorce dos mil quince pues bien hemos de partir de un principio simple pero contundente como es el principio de la razonabilidad

un simple ejemplo es la imposibilidad material de la implantación de la formación profesional básica presentada como una vía alternativa

con lo que ello supone para segregación temprana tal y como está planteada

la lomce plantea que sea impartida en centros de enseñanza con profesorado que esté dentro del sistema educativo actualmente

se realiza en centros dependientes de los ayuntamientos y de entidades sin ánimo de lucro

ni espacios habilitados para poder hacerlo y en los centros de secundaria que tienen profesorado preparado para poder impartir dicha formación no tienen ni el equipamiento necesario ni el profesorado habilitado para impartir la parte técnica

a la vista de esto parece a todas luces que resultaría imposible su puesta en marcha

desde el punto de vista organizativo como desde el punto de vista económico existen situaciones técnicas subjetivas que harían imposible su cumplimiento

ekintzetara tenemos que adoptar una posición firme nos mantenemos en la responsabilidad somos conscientes y sufrimos el hecho

no sea fruto del consenso sino de una mayoría ideológica avalada por los escaños en el congreso de los diputados

que paradójicamente solo dispone de esa mayoría absoluta la fuerza que le otorgan los resultados electorales es su principal debilidad

poder legitimar sus proyectos sin contar ni siquiera con el sector educativo

y no estamos dispuestos a apartarnos del mismo renunciando a unas competencias que incuestionablemente son nuestras acudiremos al tribunal constitucional

y no cejaremos en impulsar desarrollos propios mano a mano con el sector educativo contaremos con la experiencia y el buen hacer demostrado

junto a ellos y junto a los partidos políticos de este país seguiremos trabajando y perseverando con el firme objetivo de mantener y evolucionar uno de nuestros principales valores

y seguir trabajando los resultados nos avalan

a todos los grupos de esta cámara su apoyo para todas las medidas que acordemos con el objeto de preservar nuestro sistema de educación a los efectos de que colaboremos en un fin en el que todos coincidimos

evidentemente es lo que le tocaba hacer hoy al señor oyarzabal en esta cámara sin tener en cuenta la realidad de nuestro sistema educativo para nada

una ley para españa no para euskal herria legitimidad de la ley ha dicho legitimidad

en españa una mayoría española podemos ver el sociómetro que antes también se ha comentado en varias intervenciones

y los datos están claros un setenta y ocho por ciento

en este país eso es la mayoría de la que habla el señor oyarzabal por no hablar de las opiniones que aparecen también en dicho sociómetro sobre la asignatura de religión

externas entre otras cosas donde una mayoría aplastante de más del setenta por ciento de esta sociedad se muestra totalmente en contra

esta ley es mala pero hay que hacer otra pero en madrid hay que hacer en madrid otra ley básica dice usted

que impiden que podamos decidir aquí el sistema educativo que queremos y no compartimos esa posición qué hacer firmeza pero a cumplir la ley pero hay que cumplir la ley y no podemos dejar de mencionar que cuando usted habla de firmeza también sabemos en muchas ocasiones a qué se refiere

el discurso está bien seguramente podemos compartir muchas de las cosas que ha planteado teóricamente pero no nos podemos olvidar de algunas cosas en cuanto fue consejera

que había sido consensuado por una parte de la comunidad educativa

usted subvencionó también a los centros que segregan no dio un solo paso para asegurar

que impuso programas por decreto por no hablar también de los recortes por lo tanto en lo teórico en el discurso podemos compartir muchas cosas pero creo que tenemos que bajar también a la realidad y a la práctica de todos los días nosotros discrepamos fundamentalmente en lo que le acabo de comentar

no compartimos la idea de seguir mirando a madrid de seguir pidiendo que en cuanto el partido popular pierda las elecciones

en la cual también tendremos que pelearnos las competencias o las no competencias para este país y esa parte creemos que

beste gauza pare bat komentatu zituen orain dela gutxi apeló a la actuación conjunta en la defensa del sistema educativo vasco

que ataca a las competencias vascas en materia educativa y que tiene un marcado carácter segregador el lehendakari

en el pelotón de los más torpes de europa algo que el ejecutivo no va a permitir porque nos jugamos el futuro de euskadi

de una manera o de otra pero que se va aplicar entonces

esandako gauza bat uste dut atzo bertan elkarrizketa batean que recurran al constitucional quien crea que tiene motivos para hacerlo está bien

es más en el caso de algunos me parece estupendo dicho lo cual me parecería igual de bueno que estas comunidades aplicaran las sentencias del tribunal constitucional mahaia horretan